legebiltzarburu andrea eskerrik asko no voy a rebatir lo que ya ha sido debatido y rebatido y tampoco lo voy a hacer por no provocar tampoco

sin oportunidad de intervención a los grupos parlamentarios ante lo que puedan haber sido sus apelaciones una cuestión sí

hombre una acusación de que estemos hablando señor sémper

la misma en sentido contrario por parte de la portavoz de eh bildu de que escondemos la ley de consulta o de que no hablamos del estatuto etcétera

y hacer la cuantificación también sobre qué ha hablado y he dejado de hablar de qué ha hablado más y de qué he hablado menos sería mejor en todo caso que para evitar estas interpretaciones y estas disquisiciones entre los grupos parlamentarios y no en relación al lehendakari solamente

para abordar un diagnóstico sobre lo que es el estatus de autogobierno y cómo profundizar en él y desarrollarlo yo creo que hoy se han vuelto a

y en legislaturas anteriores también y no solamente en cuanto a esquemas sino también en cuanto a discursos

ha reconocido que ya fue presentado aquí en primavera de este año y que si venimos hoy a la fecha en la que estamos no es por un deseo del gobierno de que así haya sido

extraigo como conclusión es que hablando de lo que estamos hablando de la producción legislativa de la presentación de un programa legislativo la producción legislativa

cuenta más la seguridad de lo que hagamos en este parlamento en cuanto a producción legislativa más que en la competición de cuántos proyectos de ley

a algunas de las iniciativas en cualquier caso me quedo con lo positivo y con la disposición al acuerdo mostrado por yo diría que todos los grupos parlamentarios

euskadik behar dituen legeak adostu eta onartu ahal izateko me va a permitir por lo tanto cerrar

en primer lugar el objetivo del gobierno está recogido en nuestro programa y se centra en dos ejes de actuación propiciar el crecimiento sostenible y favorecer el desarrollo humano el programa legislativo que hemos presentado hoy se orienta por este mismo objetivo en segundo lugar tres palabras caracterizan el programa legislativo

hemos planteado las leyes que necesita este país y creemos que resulta razonable pensar que vamos a poder aprobarlas en esta cámara la presente legislatura es un programa

nuevas propuestas e integrarlas en los trabajos preparatorios de la administración y es un programa flexible la propia composición de esta cámara nos demanda esta flexibilidad porque insisto en que no queremos correr el riesgo de hacer leyes que duren lo que dura un gobierno y en tercer lugar este es el programa legislativo

haremos el máximo esfuerzo de consenso y acuerdo intentaremos como también es una máxima hacer leyes de todos por todos y para todos

para estos próximos años la relevancia de los temas que se han planteado ya por las consideraciones del propio gobierno ya por las consideraciones de los grupos parlamentarios va a requerir un esfuerzo de diálogo y acuerdo por parte de todas las sensibilidades políticas representadas en esta cámara como lo va a requerir también